nosotros hemos presentado nueve propuestas de resolución que vienen a recoger los principios democráticos que upyd siempre ha defendido y que

en el pleno de hoy pero además de recoger principios democráticos nuestras propuestas de resolución recogen propuestas concretas de actuación más allá de palabras pomposas y discursos más o menos contundentes que hayamos podido escuchar a lo largo de la mañana de hoy

hacen falta medidas que terminen por finiquitar el terrorismo de eta hacen falta que los demócratas planteemos

derrotar definitivamente a eta y es lo que básicamente proponemos en nuestras nueve propuestas de resolución por eso proponemos que este parlamento

su firme compromiso en lograr la disolución incondicional y definitiva de la banda terrorista por eso proponemos que este parlamento defienda lo que debe defender todo demócrata que defienda la legalidad vigente y el estado de derecho

y las instituciones democráticas los derechos ciudadanos y las libertades públicas como modo óptimo como modo indispensable para lograr la derrota

de la banda terrorista por eso proponemos que este parlamento renueve su firme compromiso en atender a las víctimas del terrorismo como merecen por eso proponemos que este parlamento defienda la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos

siguen sin estar resueltos y por eso instamos proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco y al gobierno de españa a que lleven a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para promover y lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos por eta no resueltos a día de hoy

al fiscal general del estado a cumplir escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo expresado en una carta que remitió a covite hace cuatro meses

especial y que se impulsarán las actuaciones necesarias para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente por eso proponemos instar

de tal forma que ninguno de ellos pueda acceder a ningún beneficio penitenciario o plan de reinserción

perdón sin haber condenado a eta y su historia criminal haberse arrepentido de los crímenes cometidos y haber colaborado activamente con la justicia por eso proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa a

el delito de negacionismo de los crímenes terroristas tal y como ocurre con aquellos partidos políticos y asociaciones afines a la banda terrorista eta que continuamente utilizan expresiones como presos políticos

a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista para justificarla como si sus crímenes no hubieran existido o fueran justificables

solicite al gobierno de españa que aplique la actual legislación en materia de política penitenciaria pero que lo haga de manera estricta no laxa como instrumento

de los delitos y por eso proponemos que este parlamento considere justa y necesaria la aplicación de la doctrina

y finalmente proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa

en su caso cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico con especial atención a la defensa de los principios democráticos los derechos y libertades fundamentales

y proponemos instar al gobierno de españa a que aplique la legislación y la doctrina del tribunal supremo del tribunal constitucional y del tribunal europeo de derechos humanos para evitar que formaciones políticas que siguen justificando o apoyando la violencia terrorista

de formaciones políticas ilegalizadas y por eso proponemos que este parlamento

a que inste al fiscal general del estado a que inicie el procedimiento de ilegalización de las coaliciones bildu amaiur y eh bildu y del partido político

como aquí se ha dicho hoy por la mañana siguen justificando las acciones criminales de eta y siguen sin condenar a eta y su historia criminal

recogen los principios democráticos que todo demócrata debería defender insisto la legalidad vigente el respeto a los derechos humanos las instituciones democráticas el estado de derecho

de los derechos humanos la defensa de los derechos ciudadanos la defensa en definitiva de las libertades públicas principios que defendemos

proponemos actuaciones concretas basadas en estos principios propuestas que están perfectamente recogidas en esas nueve propuestas de resolución

es ciertamente sorprendente la propuesta de resolución planteada por el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular

que esta propuesta de resolución no cite a eta es ciertamente sorprendente que esta propuesta de resolución que ustedes han registrado no cite a eta

que anunció el cese definitivo de la actividad armada que ni siquiera entrecomillen es ciertamente sorprendente es profundamente decepcionante y por lo tanto esta propuesta de resolución en nuestra opinión es claramente

no proponen nada concreto no proponen ninguna actuación concreta y no proponen ninguna medida concreta e insisto no nombran

y su pretensión de imponer un proyecto político totalitario

sorprendente en esta propuesta de resolución que obviamente nos ha sido entregada hace apenas una hora

a eta ciertamente sorprendente cuando creo que sí sí se cita a eta únicamente para decir que anunció el cese definitivo de su actividad

ustedes hablan de búsqueda de la paz ustedes hablan

la responsabilidad de cada cual los demócratas no tenemos ninguna responsabilidad los demócratas no tenemos ninguna responsabilidad

también de un acuerdo compartido entre diferentes sobre las causas de lo ocurrido se podrá dar una pluralidad de interpretaciones sobre la génesis

en fin como digo profundamente decepcionante y claramente insuficiente nosotros sí proponemos concretas señoras y señores parlamentarios el problema en euskadi ha sido y es eta el problema en euskadi son los partidos políticos que siguen justificando

el problema en euskadi no es que no haya paz si no que no hay libertad continua amenazante esto es el problema fundamental que ha habido en euskadi y que sigue habiendo el problema en euskadi ha sido eta en conclusión no necesitamos palabras pomposas no necesitamos discursos más o menos contundentes

actuaciones concretas para derrotar a la banda terrorista eta esto es lo que necesitamos

esto es lo que euskadi necesita y todo esto en nuestra opinión está recogido en nuestras propuestas de resolución nada más y muchas gracias eskerrik asko

el miedo escénico a que nos vean llegando a acuerdos la ciudadanía lo que espera de la clase política

ciudadanía debería pesar más que los recelos que pueda tener cada formación política para con su parroquia deberíamos y todos liberarnos del vértigo que nos produce que se dude de nuestras convicciones por el hecho de acercarse al que era

deberíamos ir convirtiendo en contrario político dejando los términos y las actitudes del pasado en el pasado

apustu irmo eta sendoa antes de terminar la presentación de estas resoluciones quisiera hacer

y todos en este monográfico supera la propia sesión parlamentaria supera a las parlamentarias y a los parlamentarios

y supera incluso al propio parlamento el tema que estamos tratando hoy aquí se enclava en el acontecer político de este país ni siquiera tiene mucha importancia el mero resultado de las votaciones

en un proceso que viene de muchos años atrás y que se encuentra en un momento crucial

que a buen seguro marcará una etapa nueva diferente a la anterior desde este parlamento podemos ayudar o dificultar podemos aportar o entorpecer pero en cualquier caso

en paz y en convivencia va a ser una realidad eso es

y cada una de nosotras deberíamos de trabajar para sacar la nariz de nuestras miserias y mirar al horizonte porque estoy segura de que lo conseguiremos

gracias señora presidenta muy buenas tardes antes de comenzar a explicar la propuesta de resolución el grupo popular ha firmado junto con el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos quisiera hacer una cuestión previa presidenta ya que

de la historia de eta ha habido un nombre que yo creo que entre los muchos que eran se ha saltado que ha sido enrique casas

y por tanto señora presidenta nos gustaría que esto fuera así recogido

desde el grupo popular hemos reivindicado la necesidad de poner en valor

para el grupo popular aquel paso aquel paso de formar parte de aquella ponencia y de trabajar en aquella ponencia no fue fácil porque no queríamos que aquella ponencia se pudiera convertir en un altavoz de aquellos que no condenaban la violencia

y ese temor si recuerdan se nos suscitó por el hecho de que se manifestara una y otra vez que esa ponencia estaba abierta a todo aquel que quisiera participar incluso desde fuera

sabíamos que ese interés de manifestar la condición de abierta

pero lo que no queríamos era contribuir con nuestra presencia a que se pudiera desnaturalizar

la violencia los diferentes trabajos llegaron a un documento que es el que hoy traemos a votación

este texto nos acerca a quienes desde diferentes ideologías compartimos un suelo ético y democrático común se trata de un texto que construye que aporta unas bases para una sociedad dolorida después de décadas terrorista señorías tengo que decirles que cada vez que releo este documento se me ocurren modificaciones en cada uno de sus párrafos tratando de acercarlo más a la forma en la que el partido popular

esas mismas ideas pero en ese momento recuerdo que es un acuerdo entre diferentes y me hace sentirme orgullosa de haber sido capaces de establecer

aspectos tan importantes como que ni una sola causa política puede situarse por encima de los principios básicos de la ética y el respeto de los derechos humanos

que el valor del respeto a la dignidad humana la persona y a los derechos humanos

o idea política el compromiso con la democracia

importantes que creemos que debían ser recogidos y que también nos parece que son ese

seguramente que algunos podrán pensar que es algo que debería ser obvio pero cuando una sociedad ha vivido tantos años de terrorismo cuando cada uno

era importante reencontrarnos y encontrarnos en estos conceptos y compartirlos supone también determinar y reconocer la responsabilidad la memoria no neutral una memoria que constituye una

ética social y política del terrorismo hablamos de la verdad hablamos del sufrimiento injusto de las víctimas y evitar la impunidad y la consecución de esa convivencia señorías creemos que fue un esfuerzo que merece la pena que en el año dos mil trece este parlamento ratifique

el objetivo del partido popular durante todas estas semanas cuando sinceramente teníamos dudas de que aquellos que también pusieron en valor y que también trabajaron en esa ponencia teníamos dudas de que siguieran creyendo que aquel esfuerzo la pena para nosotros mereció la pena

fue un esfuerzo fue un esfuerzo para todos nosotros por tanto yo quiero agradecer

nacionalistas vascos que finalmente hayamos podido

someterlo a su votación y además no ocultar de dónde viene cuál fue su origen y su origen

en este parlamento y eso creíamos que era importante recogerlo y agradecemos a los grupos que hayan tenido también la sensibilidad

hemos analizado también las propuestas de resolución del resto de grupos parlamentarios en cuanto a las propuestas de resolución del grupo upyd señor maneiro contará con nuestro voto como no podía ser de otra manera en todas aquellas iniciativas que vayan dirigidas

compartido con las víctimas que es la de esclarecer los asesinatos pendientes el de buscar la verdad la justicia y la reparación el de buscar que la justicia no mantenga algo que se ha acuñado durante estos últimos días que es

por los asesinatos también aquellas que va dirigida a reivindicaciones como colectivos como covite pero también le digo señor maneiro que no vamos a apoyar no vamos a respaldar

aquellas propuestas de resolución que tienen una intencionalidad muy clara por parte de su grupo que no se las oímos solo aquí sino que también en el congreso de los diputados y es tratar de poner en duda la determinación del gobierno de mariano rajoy

o en la aplicación del estado de derecho en toda su extensión para luchar contra el terrorismo ahí no nos va a encontrar ahí no vamos a estar

que no se están produciendo y que son profundamente injustas ahí no nos va a tener y usted lo sabe bien en cuanto a las propuestas

tratando de dulcificar y reexplicar

su compañero esta misma mañana que desde luego creo que no supone ni un antes ni un después de las cosas que hemos estado escuchando

muchos años pero claro hay cosas que realmente son sorprendentes cuando se hace referencia a algún punto

es que es una burla para la sociedad vasca es una burla

vengan ustedes a reivindicar alguna de las salidas y propuestas que se hacían

a estas alturas ahora nos vienen con soluciones

ahora nos vienen a reivindicar esas soluciones esa era la solución

cuánto tienen que explicar cuánto perdón tiene que pedir a esta sociedad por todo lo que han hecho durante estos veinticinco años para venir hoy

si ustedes dinamitaron el pacto de ajuria enea si ustedes no creyeron a partir de ese pacto de ajuria enea que luego también otros se encargaron de dinamitar cada uno siguió una dirección

y romper esa idea que se trasladaba una y otra vez a la sociedad vasca de que eta era imbatible de que

y creímos en el estado de derecho y creímos que desde la democracia se podía derrotar a eta y ahora ustedes nos vienen con estas

no solo a las víctimas es que es a la sociedad vasca por tanto lo que les pedimos

que no enmascaren más con buenismos ni

remitirse a no se sabe qué batallas para justificar todos estos años

y reconocer el fracaso de todos estos años y es duro para ustedes y mucho más duro para los que están en la cárcel y saben que no van a salir

mucho más duro pero eso es un recorrido que solo lo pueden hacer ustedes nadie más muchas gracias

gracias señora presidenta señorías los socialistas vascos el partido nacionalista vasco el partido popular hemos hecho un gran esfuerzo de

una única resolución que sintetiza perfectamente los compromisos básicos que compartimos para construir el futuro de la sociedad vasca

para asentar la convivencia democrática de nuestra sociedad es una resolución que recoge íntegramente el esfuerzo de diálogo y de consenso

que todos individualmente podríamos proponerle cambios pero precisamente su valor el valor más importante

y que recoge esos compromisos para expresar sin ambigüedades las bases sobre las que tenemos que construir nuestro futuro un futuro

un futuro para la convivencia sustentado en valores democráticos

un futuro respetando las reglas de juego que nos hemos dado y todo eso lo recoge nuestra resolución por eso yo quiero

a arantza quiroga el esfuerzo que han hecho que hemos hecho para que al final presentáramos una única resolución porque es

que la inmensa mayoría de este parlamento estamos de acuerdo sobre las bases sobre las que tenemos que construir nuestro futuro pero además la resolución contiene

asimismo recoge compromisos sobre la memoria sobre las víctimas del terrorismo parte del trabajo que hemos hecho

esta mañana pero estoy seguro que es una resolución que va a permitir que en el futuro podamos si hay voluntad por todas partes para ensanchar acuerdos para trabajar sobre un suelo que compartamos y especialmente para construir una sociedad decente en relación con las resoluciones de los demás votaremos todas aquellas que estén en coherencia con lo que los socialistas hemos defendido y hemos expresado esta mañana en el pleno en concreto

la tres y la cuatro también votaremos a favor de la resolución número dos aunque ya hemos acabado con eta y con las actividades terroristas queda conseguir que se disuelva definitivamente y de forma incondicional y sin contrapartidas y por lo tanto por eso votaremos esa resolución

porque nosotros no solo respetamos el trabajo de la justicia sino que respetamos sus ritmos de trabajo y por supuesto votaremos en contra

porque apoyamos la legislación penitenciaria apoyamos las leyes que nos hemos dado para regular nuestra convivencia apostamos por la separación y el respeto a los diversos poderes en este caso a la justicia y apostamos por el cumplimiento de las leyes y señor maneiro o usted no se ha leído la resolución que hemos presentado y le han preparado una intervención que simplemente falta a la verdad

porque la resolución contiene en la página dos referencias expresas a eta expresas y claras una donde

el veinte de octubre de dos mil doce ha abierto un nuevo panorama y un nuevo tiempo para abordar las soluciones que tenemos que afrontar en esta sociedad y además acaba diciendo

será posible con la desaparición definitiva de eta usted ha mentido hay dos referencias expresas a eta y una que es muy importante que hace referencia a que eta tiene que desaparecer yo le pediría que rectificara porque todo no vale en política usted está muy acostumbrado a la instrumentalización para intentar buscar un titular cada uno hace lo que le parece

nosotros siempre hemos defendido que en cuestiones de terrorismo en políticas de memoria de convivencia es bueno escuchar al diferente y es bueno buscar a través del diálogo el máximo consenso con ustedes parece que es imposible

por fijar su posición por encontrar un minuto de gloria que por buscar consensos y mire usted ha podido ser una persona y su grupo que han fijado posiciones muy claras y contundentes en relación con el terrorismo pero se lo diré con claridad nosotros no vamos a admitir que nos dé lecciones de cómo

de cómo combatir el terrorismo y cómo defender nuestras posiciones porque nuestra historia nos avala y por supuesto que tampoco vamos a aceptar que usted

o manipule lo que proponemos sobre todo cuando está escrito y es tan clara como la resolución que hemos presentado

porque en política es bueno rectificar cuando uno se equivoca en relación con las resoluciones que ha presentado eh bildu diré que votaremos en contra de todas ellas porque o bien inciden en los postulados

en este parlamento o simplemente recogen las posiciones absolutamente equivocadas

de los radicales abertzales en el pasado

a poder abrir ese nuevo tiempo que todos deseamos porque miren nos presentan algunas resoluciones que hacen referencia a víctimas e ignoran el trabajo que este parlamento y el gobierno vasco hemos hecho

nos presentan también otras resoluciones en concreto me interesa comentar alguna porque las demás simplemente responden a lo que son las reivindicaciones ya conocidas no de eh bildu sino de batasuna

por eso lamento que quienes formando parte de eh bildu no tengan capacidad de influencia para que las resoluciones que ustedes presentan recojan también postulados que por ejemplo ea o aralar defendían recientemente en este parlamento

la coalición les ha llevado a abandonar algunos de los principios básicos que defendían en el pasado cada uno es responsable de sus decisiones pero en todo caso me importa fijar la posición en relación

porque ustedes han presentado íntegramente el texto del

tres cosas la primera que una vez más llegan veinticinco años tarde y en fin deberían recuperar el tiempo perdido segundo que no valen interpretaciones parciales del documento de ajuria enea que formaba parte de un todo

íntegro que no se puede extrapolar los puntos de su contenido y por eso creo que deberían reflexionar sobre esto que siempre les pasa que llegan tarde siempre a casi todo y

han tomado la decisión de apostar por respetar

las reglas de juego y la legalidad miren

yo tengo que decirle que usted ha hecho un esfuerzo aquí de intervención amable de palabras bonitas para no entrar en el fondo de la cuestión para no responder a los requerimientos que reiteradamente a su portavoz le hemos hecho esta mañana le he emplazado en varias ocasiones

sobre cuestiones que para nosotros eran muy importantes yo esperaba que

desgraciadamente no ha sido así y créame que lo lamento porque las resoluciones que usted nos ha presentado inciden en las mismas justificaciones

esta mañana y en política es absolutamente necesario hablar con claridad

en momentos como este especialmente cuando estamos discutiendo cuestiones tan importantes como las que nos ocupan hoy no valen términos ambiguos o palabras

responder sobre qué principios éticos y democráticos quieren ustedes construir el futuro y no lo han hecho y eso es básico a la hora de poder avanzar en este país y créame que lamento esa falta de concreción y también lamento la falta de coraje o la valentía para contestar algunas de las cuestiones que sería bueno que lo hicieran y no lo han hecho porque desde luego le permitirían a ustedes ser más creíbles

cuestiones que han planteado mire no ha sido posible llegar a acuerdos con ustedes porque simplemente ustedes no han querido por lo que parece que usted ha dicho contestar algunos de los requerimientos básicos

y parece que tampoco quieren por lo que ha dicho porque no lo van a votar compartir los principios básicos insisto los principios básicos

el pp y los socialistas cada uno es responsable de sus decisiones pero yo simplemente le pediría que no nos echaran la culpa a los demás de su incapacidad

poder situarse en un nuevo tiempo y además le diría que no nos pida a los demás que flexibilicemos los principios básicos que defendemos

de defender lo que en democracia es básico y los socialistas nunca lo vamos a hacer eskerrik asko

sí gracias presidenta señor egibar señor pastor

yo les digo que en nuestra opinión esta propuesta de resolución que ustedes plantean es insuficiente lo he dicho antes

con todo el respeto a aquellos partidos políticos

que se han venido enfrentando durante años al terrorismo de eta con todo el respeto partidos que efectivamente han sufrido durante décadas las acciones criminales de eta con todo el respeto en nuestra opinión

es insuficiente y obviamente porque es una obviedad esa propuesta de resolución no recoge aquellas propuestas de resolución aquellas medidas

indispensables aplicar para derrotar definitivamente a eta no pongo en cuestión en absoluto faltaría más su compromiso democrático nunca lo haría

su propuesta de resolución no recoge las actuaciones que pensamos desde upyd son necesarias para derrotar a eta actuaciones y propuestas de resolución

ni a ningún otro gobierno propuestas en las que creemos firmemente y pensamos que son indispensables y que como saben ustedes siempre las hemos defendido

lecciones en absoluto yo les digo que nuestras propuestas son concretas y plantean lo que nosotros pensamos que debe hacerse

hay que tomar decisiones y nosotros planteamos una serie de decisiones en las que firmemente creemos creo que en mi primera intervención he dicho que se cita a eta únicamente al comienzo creo que lo he dicho así y que efectivamente a lo largo de la propuesta de resolución se obvia posteriormente citar

como el problema que tiene y que ha tenido siempre euskadi creo que lo he dicho así se cita se cita al comienzo lo he dicho pero luego hay tres páginas más en las que no se cita y en nuestra opinión insisto es insuficiente el respeto con todo el reconocimiento que ustedes quieran a la labor que han desarrollado miles de cargos públicos de sus diferentes partidos políticos en todo caso no se preocupen por upyd

el suelo ético el suelo democrático lo tenemos muy claro no tengan ustedes ninguna duda también es verdad que no necesitamos sinceramente y con toda la humildad del mundo no necesitamos ninguna ponencia para saber cuál es el suelo ético y el suelo democrático de los demócratas

es una obviedad cuál es el suelo ético de los demócratas la legalidad vigente el respeto a los derechos humanos el respeto a los ciudadanos pero ya digo que nuestras propuestas plantean concretas y es obvio también que su propuesta de resolución no recoge ninguna de ellas insisto propuestas concretas en las que creemos y que no se plantean para dañar a ningún gobierno de hecho algunas de estas

el señor carlos urquijo las ha venido defendiendo

estas son nuestras propuestas de resolución creemos que son las necesarias para derrotar definitivamente a eta y no haya ningún tipo de impunidad

por cierto no es que eh bildu llegue tarde o llegue veinticinco años tarde

no ha llegado eh bildu está donde siempre estuvo justificando las acciones de eta por lo tanto no estoy de acuerdo con alguna afirmación que ha realizado algún portavoz que ha venido a decir que llegan tarde no eh bildu no

no ha llegado y está donde siempre estuvo y hoy hemos podido escucharles en todo caso ahí están nuestras propuestas de resolución

era miope y sobre todo no era operativo para la solución como se ha demostrado veinticinco años después sigue el problema por lo tanto no no era la solución la verdad es que me resulta un sarcasmo tener que oír los grandes esfuerzos los esfuerzos ímprobos que se han hecho

y sin embargo no se reconocen los esfuerzos hechos por los demás es un sarcasmo que se hable de hablar claro hablar con claridad

señora presidenta la verdad es que no pensaba intervenir pero creo que merece la pena puntualizar un par de cosas yo no sé señor

no lo tengo muy claro su problema con este texto que sinceramente

que no se menciona más veces a eta si usted hubiera participado en esa ponencia nos hubiera ayudado seguramente con su voz con su voto con su fuerza a que hubiéramos incluido más veces si ese era su problema la palabra eta

me parece que es una falta de respeto y yo le animo a que lea ese texto y nos diga con qué parte de ese texto

y no lo ha dicho no lo ha dicho otra cosa

señora mintegi vamos a ver usted dice que

para dejarles a ustedes fuera usted sabe que está faltando a la verdad usted sabe que sí usted sabe que está faltando a la verdad porque sabe

que nos ha planteado que ahora quería votar por ese acuerdo

su problema no es ese su problema es que hoy

tiene que reconocer que se equivocaron una vez más que llegan tarde una vez más y que un partido político llegue tarde a los acuerdos

puede tener consecuencias dentro de su representación

los que le votan le castigan porque no ha llegado a tiempo a un acuerdo pero es que en su caso

y eso tiene una consecuencia en todas las víctimas que se han leído esta mañana ustedes tendrían que reconocer que se equivocaron que fueron tremendamente injustos en todas sus manifestaciones de la legislatura pasada y aquí hicimos un esfuerzo y lo he puesto en valor hicimos un esfuerzo

pero llegamos a tiempo y ustedes no y desde el partido popular nos hemos empeñado en que se dijera de dónde venía ese acuerdo

de justicia con aquellas personas que fueron valientes en un momento determinado con aquellos grupos que fuimos valientes en un momento determinado y que ustedes estaban a otras cosas estaban a sus intereses porque siempre sus intereses los han puesto por encima de los intereses de la sociedad vasca esa es la realidad y usted aquí puede contar lo que quiere pero esto es lo que hemos vivido

que apostarán por decir de dónde viene este acuerdo porque nosotros también tenemos que explicar

y como palabras que para nosotros son importantes las reformulábamos de otra manera para poder llegar a un acuerdo entre todos

en este parlamento no sabemos qué segunda parte tendrá eso será algo que se tendrá que decidir más adelante pero que es importante que hoy este sea el acuerdo del parlamento y coincido con usted señor egibar esa es la noticia hoy esa es la noticia y una vez más ustedes se quedan fuera pero por lo que he dicho porque ustedes quieren

gracias señora presidenta señor maneiro usted dice que la propuesta de resolución que presentamos conjuntamente

pero no le he oído decir y me alegro que en todo caso comparte los principios básicos que se recogen en la misma me dice que sí me alegro de que sea así porque

cuando le votemos alguna de las resoluciones que usted plantea espero que en fin en el futuro pueda usted sumarse al consenso y pueda entender que estamos haciendo un esfuerzo también para incorporarle a usted

creo que debería abandonar esa actitud que mantiene muchas veces del todo o nada porque

defender sus posiciones y que algunas de las que usted defiende se puedan incluir en los textos que consensuamos porque cuando no se participa en el diálogo que otros propiciamos es muy difícil poder recoger sus sugerencias

creo que es importante que le diga que lamento que usted no reconozca su error de su primera intervención y no rectifique en política

es también importante y es evidente que la resolución contiene términos referidos a eta y la palabra eta la referencia a eta está en la resolución

mire usted dice que ajuria enea no era la solución pero veinticinco años después

una propuesta de resolución referida al punto diez por lo tanto me reitero en la idea primero de que llegan tarde a todo también

precisamente presentar solo ese punto es la demostración más clara de que ustedes años después recogen aquello que

para ustedes fuera sacándolo de contexto del contexto temporal en que se dio el acuerdo de ajuria enea

y en todo caso lo más importante es que ustedes no lo firmaron una vez más tarde y ustedes

a casi todos los pactos o bien porque no los firmaron o bien porque su actitud de cerrazón impidió que se firmaran

y como alguna de sus resoluciones hace referencia a algunos de ellos

esta cuestión ustedes han llegado tarde no solo a ajuria enea sino que en loyola

imposible que hubiera acuerdo ustedes hicieron imposible que hubiera acuerdo en otros foros

dialogaban con ustedes como eta hizo imposible todos los procesos abiertos de diálogo para acabar definitivamente con el terrorismo y yo

que creo que es importante hoy espero sinceramente que una vez más no pierdan el tren del diálogo y del consenso que proponemos en nuestra resolución y que se va a plasmar como principios básicos en una ponencia que se constituirá en este parlamento sobre paz y convivencia espero que no pierdan el tren porque seguramente dentro de muchos años les pasará lo mismo que les pasa hoy que algunos de los contenidos de esos acuerdos

no es que hay votos diferentes pero los demás también tenemos votos diferentes

las cinco primeras van por separado y las otras